la situación que atraviesan las industrias culturales de euskadi es muy complicada derivada así de la crisis económica pero

y al cambio de los hábitos culturales de la propia sociedad

es por ello que le pedimos señora consejera nos explique las líneas generales de sus políticas de apoyo a las industrias culturales de euskadi aldez aurretik eskerrak emanez

se acuerdan siempre con el sector siendo los comités de selección profesionales del sector en el ámbito de la edición literaria la puesta en marcha de la biblioteca digital eliburutegia

en el ámbito del cine se ha puesto en marcha políticas novedosas e apoyo a la coproducción

con apoyos logísticos en el acceso a los mercados y formación especializada a nuestros productores hirugarren inbertsio pribatua erakartzeko zerga sistema

cuarta línea acceso a la financiación con el fin de acercar los sectores cultural y financiero y garantizar al sector cultural las mismas oportunidades que pueden tener el resto de las empresas se ha trabajado intensamente con elkargi referencial en el apoyo financiero dirigido a empresas

y contamos además con el apoyo de toda la estructura desde la dirección general como se pudo ver en el zinemaldia

con quienes hemos lanzado una convocatoria de diagnóstico y asesoría financiera para empresas culturales esta iniciativa ha tenido muy buena acogida eta bosgarren ildoa

eta ertzaintzak jasotako kritikak pero admitido y

a debate sinceramente me parece que no es lo más adecuado por respeto precisamente a la persona afectada y vuelvo a repetirle lo que ya dijimos en su momento

en cuestión fue un error y fue algo involuntario dentro de esas rutinas de renovación de la página web

que no debía de haberse incluido la foto de una persona con nombre y apellidos como parte de una lista policial de personas buscadas por su pertenencia a eta cuando ya es verdad no existía ningún tipo de requisitoria

búsqueda sobre esta persona aunque sí lo hubiera existido en el pasado pero que ahora insisto no existía quiero aclarar que la página web solamente

recogía ninguna otra información ninguna valoración ninguna asignación de ningún tipo de responsabilidad sobre esta persona inmediatamente en cuanto fuimos conscientes del error se rectificó aceptamos

y sobre todo lamentamos como no puede ser de otra manera el daño que se le ha causado a esta persona eskerrik asko beltrán de heredia

por respeto a la persona pero por respeto a la persona también se podría haber dignado a ponerse en contacto con él para transmitirle error y para también preocuparse por los evidentes perjuicios

pero porque además se le estaba poniendo a los pies de los caballos de operativos o de procesos judiciales arbitrarios y con eso en este país señora consejera no se puede jugar sabemos que algunos periodistas por el contrario algunos de los que hicieron la publicación de esa noticia sí que se han puesto en contacto con peio sánchez

y se ponían a la disposición de sánchez mendaza para solventar el perjuicio que le hubiesen podido

que tiene el gobierno me dice usted que desaparece la foto y me dice que es una rutina pero yo le quiero preguntar cómo funcionan

es decir una persona que ha cumplido la condena en francia que recibe notificaciones del tribunal de paris y de la audiencia nacional de madrid en su domicilio resulta que los servicios de

absolutamente nada sobre esta persona no saben que tiene liquidadas todas las cuentas con la justicia no saben que tiene un contrato de trabajo legal vigente en iparralde no saben en la seguridad social no saben que reside en iparralde pero viaja

que ha participado en actos políticos en comparecencias políticas de forma absolutamente normalizada y lo que yo le pregunto es no toman ustedes absolutamente ninguna medida frente a esta chapuza cómo lo van a corregir

componentes han cesado a sus responsables o como me temo no han tomado absolutamente ninguna acción

yo creo que se desacredita sola con este tipo de actuaciones yo creo que son ustedes los que la desautorizan con estas prácticas

eskerrik asko bueno insistirle como departamento ya hemos reconocido

dentro de las rutinas de renovación de la página web

se ha dejado constancia que se rectificó inmediatamente en cuanto se tuvo constancia de ello

ningún daño a esta persona que no hubo voluntad de causar daño y prueba de ello también es que se hizo llegar a esta persona a la persona afectada

que eran conscientes de lo ocurrido que asimismo

a las informaciones que habían salido publicadas sobre este tema las informaciones que relacionaban las fotos con la página web de la

y además que se hacían otras consideraciones en relación a interpretaciones confusas contradictorias incluso fuentes citando fuentes no especificadas le dijimos y lo dijimos y lo volvemos a decir insisto le dijimos lo dijimos y

lamentamos insisto lamentamos la publicación de esta foto

un proceso rutinario pero lamentamos también y por encima de todo

esta persona puede ejercitar sus derechos a la reclamación de daños que
se le hubieran podido causar eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzarkideok egun on guztioi señora consejera error sobre error y nunca enmendar la mayor

la historia del mandato de la actual dirección de e i te be no es una impresión de los socialistas es un dato que ustedes mismos están constatando porque a causa de los errores de la dirección de e i te be

como propias todas y cada una de las deficiencias en la gestión de este servicio público

de recursos humanos pero hoy voy a referirme a las que tienen que ver con decisiones

sobre las que nunca se piden responsabilidades y que exigen rectificaciones por parte de ustedes del gobierno señora consejera tiene que ver con posicionamientos políticos siempre de corte nacionalista y demasiadas veces relativas a algo tan sensible como es el tratamiento

como instrumento de acción política sin ir más lejos hace dos semanas el propio lehendakari tuvo que

y asumir lo inoportuno de la emisión del documental ventanas al interior

tuvieron que rectificar el plan estratégico en octubre del dos mil trece tuvieron que dar explicaciones

relativa a gure esku dago en enero de dos mil catorce

en febrero de dos mil catorce sobre manipulación informativa en octubre de dos mil catorce sobre la expresión presos políticos en noviembre de dos mil catorce y esta se ha vuelto a repetir hace dos semanas sobre una entrevista a mikel zubimendi en febrero de dos mil quince

unas declaraciones suyas en esta misma tribuna al respecto de alguna de las cuestiones que he comentado dijo usted

y cuando se dan errores toca sencillamente reconocerlos analizarlos

y lo manifiesto con absoluta sinceridad como ya lo he hecho anteriormente nadie es perfecto todos podemos cometer errores todos cuando se hace algo mal hay que reconocerlo y hay que intentar que no se repita pues eso señora consejera hay más ejemplos pero yo creo que estos son suficientes

han tenido que reconocer errores inoportunidades o poner otro tipo de excusa para salir del paso consejera le repito error más error así lo asumen ustedes

a una directora cuyo cese ha pedido este parlamento creo que son casos más que suficientes para que ustedes se planteen hasta dónde pueden llegar sin pedir responsabilidades y sin exigir

de estas situaciones por ello le formulo la siguiente pregunta qué medidas cree usted

de e i te be para que no vuelvan a repetirse los errores en los que han incurrido
el ente de radio televisión pública vasca muchas gracias eskerrik asko

señor unzalu en la justificación de su pregunta hace usted alusión a diversas situaciones que la dirección de e i te be ha debido gestionar a lo largo de esta legislatura y las califica usted de errores

que está usted reduciendo la gestión de todo un grupo de comunicación

emisión gestión de recursos humanos control presupuestario etcétera a la mínima expresión considero que no es proporcionado en primer lugar critica usted la gestión de e i te be en relación a la presentación del texto de plan estratégico

recoge expresamente el reconocimiento de la vulneración de los derechos causado fundamentalmente por eta y el compromiso de

con las que no se está de acuerdo sin embargo debemos aprender a respetarlas suponen dar voz y ceder espacio a todas y cada una de las ideologías

ni comparten ni tienen porque hacerlo el punto de vista reflejado en todos y cada uno de los contenidos emitidos

sería impropio sería una injerencia inaceptable beraz

sí mire señora consejera efectivamente en el plan estratégico

que han tenido que hacer y con todo el respeto señora consejera mire cuando yo he puesto gure esku dago

no estaba refiriendo a la información que se dio

página web de e i te be aparecía un link para inscribirse en gure esku dago y ustedes tuvieron que rectificar a eso me estaban refiriendo y usted me contesta sobre la información que dijimos lo que pensábamos

el alcance de ella vale entonces cuando

que iban a poner medidas para no cometer errores usted

que pongan en marcha lo que usted misma aquí mismo dijo he leído textualmente sus declaraciones en esta tribuna mire usted

tuvieron que rectificar muchas veces y yo creo que la ciudadanía vasca no se merece eskerrik asko

señor unzalu he de decir en rasgos generales y salvo alguna situación puntual que efectivamente ha sido reconocida públicamente por la propia dirección a veces no es

en defensa de un principio de igualdad de la diversidad de opiniones y de la pluralidad creo que

gracias señora presidenta buenos días a todos señor lehendakari es obvio que el terrorismo yihadista está atacando duramente nuestra sociedad
los atentados de paris de mali de egipto y de túnez así como imágenes

muestran el aspecto más cruel del terrorismo yihadista estamos ante un terrorismo con características diferentes

y por tanto podemos compartir que su forma de prevenirlo y de combatirlo también tiene que ser diferente son diferentes los modos

el terrorismo yihadista como todo terrorismo intenta implantar su proyecto totalitario en este caso utilizando la religión como sinónimo de totalitarismo y como enemigo de cualquier planteamiento democrático pero como todo como el terrorismo que hemos padecido durante muchísimo tiempo

igual de fanático igual de enemigo de cualquier planteamiento democrático por eso sorprende que quien es un responsable de este gobierno haga declaraciones como las que hizo el viceconsejero de seguridad en la concentración celebrada en paris con motivo de los atentados del trece de noviembre entre otras cosas

yo le quiero decir señor lehendakari que eta respetaba el entorno qué es respetar el entorno porque igual de grave es matar a cien personas a la vez

cometer masacres también ha cometido masacres como la de hipercor

qué es respetar el entorno porque este lunes el veintitrés se cumplieron catorce años del asesinato de los

de once cinco y uno año el de javier mijangos un bebé

respetó eta su entorno este asesinato fue presenciado

respetó ahí el entorno por eso le quiero preguntar señor lehendakari cómo valora estas manifestaciones de un importante cargo de su gobierno

debate artificial que desde luego no beneficia para nada al clima de preocupación que vive la ciudadanía con los últimos atentados nadie nadie desde luego no el viceconsejero de seguridad ha pretendido comparar ni minimizar los efectos de ninguno de ellos ni los terrorismos presentes ni los terrorismos pasados no tiene sentido entrar en disquisiciones públicas

sí tiene en cambio lugar el que se hagan análisis técnicos para aplicar al presente las medidas de prevención que fueron eficaces en el pasado de hecho ayer lo hicieron técnicos policiales en las jornadas que celebraron en san sebastián o que celebraba en san sebastián covite

fue de lo que habló el viceconsejero en la plaza de la republica en parís en el contexto efectivamente del homenaje a las víctimas de los últimos atentados en parís

pero también ante las dudas que generó la noticia en los titulares que todos pudimos leer fue el propio viceconsejero el que aclaró el sentido de su conversación declaraciones que también usted pudo leer al día siguiente tratar de mantener este debate

más de crítica al gobierno yo creo que está absolutamente fuera de lugar

actual se convierte automáticamente en desconsideración hacia las víctimas y en desconsideración hacia la preocupación que tiene la ciudadanía por la deriva que están tomando

señora consejera las palabras textuales fueron eta entre comillas intentaba respetar el entorno pero a estos no todo les da igual les da igual y se llevan todo por delante y su enemigo es todo el que no piensa como él acaso eta no utilizaba esto mismo es verdad que son diferentes y eso lo he dicho y a lo mejor policialmente hay que atacarlos de forma diferente pero eso no quiere decir

todos los terrorismos sea el de eta sea el del gal o sea el yihadista deben tener la misma consideración y el mismo rechazo

que ha sufrido en carne propia los ataques terroristas de una banda diga que esa banda respetaba el entorno

señora consejera no se entienda que se pueda dar una consideración distinta a unos terroristas porque llevan txapela y capucha que a otros que llevan turbante el terrorismo es

igual proceda de donde proceda es igual de totalitario y la contundencia en el rechazo y en la definición de su acción fanática debe ser la misma todos debemos luchar no solo por evitar actos terroristas sino también por la deslegitimación del terrorismo y flaco favor hacemos

intensidades de reproches en función del color que tenga el terrorismo hay que ser cuidadosos y más cuando se tiene una gran responsabilidad como la que tenía viceconsejero y cuando se hagan declaraciones públicas ahí sí que hay que ser respetuosos con las víctimas del terrorismo y estas créanme no lo fueron en absoluto

insisto señora llanos pretender mantener este debate artificial no es bueno ni para las víctimas

por el terrorismo alimentar este debate absolutamente artificial pretende traernos y hacernos creer que

y en la lucha contra el terrorismo y en el apoyo a las víctimas pretende hacernos creer que usted es no sé la

pero esto poco poco ayuda al clima de entendimiento que requieren estos temas eta fue lo que fue

fueron lo que fueron por suerte estamos hablando hoy en pasado

cómo no el apoyo a las víctimas desde luego sin ningún tipo de ambigüedad y esto es a lo que nos debemos hoy la máxima preocupación es la lucha antiterrorista contra el yihad contra el yihadismo internacional tenemos la obligación

hacemos a la causa con estos debates artificiales sobre todo con interpretaciones de interpretaciones con el único objetivo de competir políticamente

es que inmediatamente vamos a tener que responder a otra pregunta similar que va a plantear upyd eskerrik asko eskerrik asko

maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta buenos días señora consejera

que estamos en la obligación de controlar la acción del gobierno y efectivamente estar atentos a todos lo que ustedes hacen y dicen

a preguntar por unas declaraciones polémicas de un dirigente en este caso del propio

extraordinariamente graves van a pedir perdón por las declaraciones de este viceconsejero porque efectivamente las víctimas están indignadas las víctimas están indignadas y por lo tanto lo mínimo que deberían pedir ustedes es disculpas efectivamente la pregunta efectivamente es la misma comparte usted las declaraciones del viceconsejero cuando dijo que todo es terrorismo pero

cuándo ha respetado eta el entorno general cuándo

en vic en hipercor en la te cuatro cuándo ha respetado eta el entorno general no pueden ser ustedes algo más sensibles en relación a las víctimas del terrorismo

no pueden ustedes pedir perdón no pueden ustedes asumir sus errores no pueden respetar la acción de los grupos de esta cámara que intentan recordarles cuáles son

no tiene el valor de responder a esta pregunta otra vez se esconde eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

lo que está claro señor maneiro es que el terrorismo de eta y el terrorismo yihadista son diferentes en cuanto a que marcan objetivos diferentes

estos días atrás dolores delgado la fiscal de la audiencia nacional que coordina la lucha contra el terrorismo yihadista ni de esta ni de ninguna otra declaración del viceconsejero de seguridad puede deducir nadie insisto nadie lo que usted está planteando y lo que usted ha planteado

decir afirmar como usted lo hace que con sus declaraciones el viceconsejero de seguridad desprecia el dolor de las víctimas de eta al intentar minimizar y banalizar lo que representó el terrorismo de eta

absolutamente fuera de lugar y sobrepasa todas las líneas rojas de cualquier debate político en democracia señor maneiro yo comparto todos los días día a día con el viceconsejero los análisis que en términos de

de seguridad se realizan y realiza la ertzaintza y le aseguro

del falso debate que usted sigue alimentando en beneficio político propio eskerrik asko beltrán de heredia andrea

sí señora consejera sí señor lehendakari ustedes desprecian el dolor de las víctimas

a eta en los últimos minutos y en respuesta a estas preguntas es que eta fue lo que fue eso es lo único que usted se ha atrevido a decir ciertamente triste y ciertamente lamentable mire el viceconsejero y usted misma y el señor lehendakari deben saber que existen categorías absolutas y categorías relativas

y sí admiten las segundas los ejemplos son diversos así mezquindad o ser viceconsejero son graduables uno puede ser ocasionalmente un mezquino o un viceconsejero pero hay categorías que no pueden atenuarse como son el asesinato uno o es un asesino o no lo es nadie es un poco asesino o criminal

es la categoría absoluta no hay asesinos por lo tanto que respeten el entorno al revés el entorno es su enemigo todos somos

del terrorismo a todos nos buscan y por lo tanto esto es lo que debería decir usted y lo que debería haber dicho el viceconsejero no intentar vendernos la idea de que hay terrorismos peores y terrorismos mejores o menos malos esto es lo que vino a decir el viceconsejero y si se equivocó un error lo que tiene que hacer es pedir disculpas y no lo ha hecho y usted tampoco lo ha hecho y ataca a la oposición en lugar de decir efectivamente se expresó mal no quiso decir lo que dijo pedimos disculpas las víctimas merecen todo nuestro respeto no

de decir eso en fin lo único cierto por lo tanto es que el señor viceconsejero y usted misma con su respuesta ha olvidado en fin respetar

y el dolor de las víctimas memoria y dolor que no entiende de grados ni disculpas

y que deberían conformar la base emocional de un cargo público y de cualquier dirigente de este gobierno falta de respeto absoluto otra vez hacia las víctimas del terrorismo

pida disculpas ahora diga que fue un error y que las víctimas merecen todo su respeto hágalo puede hacerlo

qué triste señor maneiro qué triste qué triste
qué triste a ver mesedez isiltasuna poner en duda a estas alturas el compromiso

con la lucha contra el terrorismo y el compromiso con las víctimas de este gobierno qué triste qué triste qué triste mire

comentó lo que comentó aclaró lo que aclaró hacer interpretaciones como le he dicho de interpretaciones a nada conduce intentar sacar rédito político propio es verdad que el terrorismo yihadista lleva mucho tiempo segando víctimas segando vidas y sembrando terror y lo sigue haciendo con métodos y prácticas diferentes

y ese es el terrorismo que más nos preocupa hoy ese es el terrorismo que más nos preocupa hoy a raíz de esta polémica precisamente mire le voy a recordar

el colectivo de víctimas del terrorismo le dirigió una carta al viceconsejero carta con la que compartimos dos cosas por una parte que hoy más que nunca es importante destacar que el terrorismo ataca a todo lo que no comulga con sus intereses intereses particulares o bien ideologías en segundo lugar decía que debemos ser cuidadosos

análisis de nuestras declaraciones en los medios de comunicación con el impacto que esas declaraciones puedan causar no solo en las víctimas del terrorismo sobre todo en generaciones futuras señor maneiro absolutamente de acuerdo con esas reflexiones

bueno me parece que es de surrealismo político total y yo creo que con esta actitud usted mire usted se autolimita en su capacidad precisamente
para colaborar en la convivencia de las generaciones futuras y para comprender el dolor de todas las víctimas eskerrik asko

berriro buenos días de nuevo señor lehendakari espero que después de esta interpelación usted no me califique ni de robin hood ni que que este grupo presenta esta interpelación con un interés ni electoralista ni partidista sino fruto de algo que ya hemos manifestado y es la gran preocupación por los momentos que estamos viviendo el viernes trece toda europa

quedaba impactada viendo cómo la gravedad de los acontecimientos de los ataques terroristas que estaban sucediendo en paris aumentaba por minutos a ello

egipto túnez y ante este escenario de horror la respuesta ha sido unánime todas las instituciones todas las fuerzas políticas todos los ciudadanos debemos estar unidos para hacer frente a ese fanatismo

a quienes quieren destruir esos espacios de convivencia y de libertad

no podemos quedarnos al margen en esa respuesta de unidad que la sociedad internacional está exigiendo a la política y a los políticos en un momento

no puede ser que los vascos no nos sumemos como le decía los últimos atentados de paris del trece de noviembre y los posteriores en mali egipto o túnez no hacen sino redoblar

esa es la más inmediata y la más importante respuesta que la política puede ofrecer a una situación como la actual cerca

los partidos políticos en euskadi en esta cámara deben debemos ofrecer unidad política ir de la mano y plantarnos juntos

firme y democrática por encima de ideas por encima de intereses por encima de estrategias unidad política para rechazar el terrorismo

para dar una respuesta política y legal a las fórmulas que puedan adquirir la amenaza del terrorismo esa es la mejor respuesta democrática y eso es lo que precisamente toda la sociedad en su conjunto está demandándonos a los responsables políticos estos días

porque en este parlamento en esta misma cámara usted ha apelado a esa unidad democrática

porque por desgracia los vascos hemos sufrido en propia carne las consecuencias de la amenaza terrorista

algunos quizás porque siguen todavía sin condenar ese pasado terrorista porque siguen sin querer ver la realidad de ese cruento pasado porque siguen queriendo tapar su silencio vergonzoso no quieren que se haga la más mínima referencia a que ese pasado exista pero ese pasado ese pasado está ahí y ese pasado es necesario reconocerlo y en ese pasado pudimos ver que lo importante lo fundamental es la unidad de los demócratas en la lucha contra eta unidad para combatir

que el gobierno vasco mantiene más de una vez ha sido usted quien ha reclamado la necesidad de actuar unidos

de los vascos por tanto sabe bien de lo que hablo y sabe bien del valor como decía que tiene esa unidad de acción democrática

para no ceder al chantaje y a la amenaza terrorista porque ha sido precisamente esa actitud la que mejor ha contribuido a la derrota del terrorismo en nuestra tierra a la derrota de eta esa unidad de todos los demócratas

por eso cuesta tanto por eso les cuesta tanto a los vascos entender la posición de su gobierno y

su poca disposición a sumar en una cuestión en el que el valor de la suma multiplica porque la experiencia

también a usted y también a su partido y darnos cuenta que solo desde la unida política encontraremos una respuesta certera y eficaz en la lucha contra el terrorismo

de que la respuesta que seamos capaces de ofrecer en una situación como la actual

a ojos de nadie y usted debiera de ser consciente de ello y actuar con la responsabilidad que le corresponde responsabilidad de situar a euskadi de situar a los vascos en la vanguardia de la sociedades europeas que apuestan

responsabilidad para que en euskadi también vayamos juntos con el resto

y contra el terrorismo por desgracia como le decía nos ha tocado convivir durante mucho tiempo con el daño que provoca una organización terrorista

está dispuesta a llevarse todo por delante con la fuerza

en esta trayectoria como le decía hemos podido comprobar el enorme valor que la unidad política

para debilitar la propia amenaza terrorista no caben excusas no caben excusas para pelear

de la unanimidad entre todos los demócratas no cabe enredarse en cuestiones que nada nada tienen que ver con el objetivo más importante que tenemos como representantes públicos en estos momentos tomar medidas desde la unidad que reduzcan

y evitar atentados terroristas yo estoy convencida

con disposición para estar en el acuerdo político que el conjunto de la sociedad internacional nos está exigiendo y demandando en estos momentos esa fotografía conjunta de todos los demócratas en euskadi también es posible porque puede haber diferencias en otras cuestiones pero en esta no caben

cerca de doscientos personas asesinadas por la barbarie terrorista en quince días no cabe otra respuesta

no se puede tolerar que se pisoteen los derechos de las personas de esa manera

más viernes trece como el que sufrimos en paris hace quince días no podemos tolerar que en nuestra sociedad vayan ganando espacio aquellos que tienen desprecio hacia la vida humana aquellos que lo único que quieren es destruir los cimientos de nuestra sociedad

mantendremos muchas diferencias porque precisamente eso significa el debate democrático hablar y dejar hablar respetar pero a la hora de plantarle cara al terrorismo a la hora de defender la democracia estar juntos porque esa constituye nuestra fuerza principal esa es la mejor manera que tenemos de decirle a los de las pistolas y las bombas que somos muchos más y que no estamos dispuestos a someternos a su dictadura

y desde luego esa experiencia no la podemos olvidar no debemos olvidar que el pacto el acuerdo el entendimiento la unidad entre todos los partidos democráticos frente a eta fueron actitudes decisivas para combatir el terrorismo

que tiene muchos años pero cuyo espíritu cuyos postulados siguen con plena vigencia el gobierno de la comunidad autónoma contando con el apoyo activo de los representantes del pueblo vasco está llamado a encabezar toda acción política y social

que lo conoce pertenece al pacto de ajuria enea fue aquel un acuerdo importante en euskadi vino a demostrar que todos los vascos y todas las instituciones vascas

al terrorismo unirse también con el gobierno de españa urgida la colaboración internacional para la prevención de atentados y la persecución de sus autores

por las libertades y contra el terrorismo en el mismo también se ponía de manifiesto que combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos no se sumaron a ese pacto en febrero después de que el fanatismo acabase con la revista satírica charlie hebdo se gestó el pacto contra el terrorismo yihadista ustedes tampoco

por ello yo le quiero preguntar como máxima autoridad del gobierno vasco qué medidas va a adoptar para evitar que el terrorismo yihadista pueda anidar en esta tierra y evitar ataques terroristas va a liderar el proceso de acción coordinada entre los partidos políticos va a liderar la incorporación de euskadi

ya definitivamente lo que durante toda su intervención estaba ocultando lo del pacto antiyihadista y la apelación a la suma al mismo del partido nacionalista vasco

para participar dentro del ámbito de sus competencias en cuantas medidas haya que adoptar para evitar el desarrollo de gérmenes fanáticos

esta es la interpelación señora llanos bien quiero comenzar mi primera intervención dejando clara la posición del gobierno vasco en la lucha contra el terrorismo yihadista radical estamos actuando en todos los ámbitos de nuestra competencia en todos los ámbitos de nuestra competencia prevención seguridad integración social educación cooperación solidaridad conozco muy bien el texto del pacto antiyihadista lo conozco y sé

en lo que es el ámbito de mis competencias o de las competencias del gobierno vasco

las instituciones y todos los partidos políticos vascos hemos rechazado y condenado los atentados cometidos en las últimas semanas tanto en europa como en áfrica

han sido acontecimientos que nos han llenado de dolor y consternación

y sus personas allegadas hemos participado en concentraciones públicas convocadas con el objetivo de extender la concienciación contra el terrorismo

y la cultura de la paz y señora llanos las convocatorias han sido comunicadas

en aras a esa unidad han sido comunicadas a los máximos representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria en el parlamento vasco han sido comunicadas a los máximos representantes institucionales de la comunidad autónoma del país vasco diputados generales

presidenta del parlamento y las han sido comunicadas por mí en persona y lo pueden atestiguar

otorgo especial importancia a esta respuesta es esencial transmite la fortaleza moral y ética con la que avanza nuestra sociedad

un país como el nuestro que ha padecido el dolor y las consecuencias del terrorismo debe ser solidario y comprender la situación que otros pueblos viven cuando sufren acciones terroristas esta solidaridad

por la sociedad vasca una solidaridad sentida y que parte del convencimiento de que euskadi no es ajena al terrorismo y las expresiones de violencia radical

en el comunicado de convocatoria a la primera de las concentraciones tras los atentados en parís siempre nos sobresalta más

responde también a un principio de igualdad y así lo hemos querido manifestar

tengamos la capacidad de compartir unos principios y una sólida base ética y estoy seguro de que ustedes no dudan de las convicciones democráticas y el compromiso ético del lehendakari del gobierno vasco o del partido nacionalista vasco porque si ustedes plantearan esta duda

ajeno a todo lo que es la realidad política mire la primera medida que ha emprendido y va a seguir emprendiendo nuestro gobierno parte del rechazo total a cualquier violencia y terrorismo comenzando por el que estamos sufriendo en europa con el yihadismo radical esa es la misma actitud que hemos mantenido en el pasado con el terrorismo de eta un convencimiento que ha llevado al gobierno vasco a combatir el terrorismo y a la ertzaintza

esa misma actitud ese principio de responsabilidad con la sociedad a la que debe proteger

ahora contra el terrorismo yihadista radical y antes contra el de eta en el ámbito de la prevención y la seguridad estamos colaborando con el resto de cuerpos policiales y hemos planteado los protocolos necesarios para prevenir y tratar de evitar cualquier ataque terrorista en euskadi la ertzaintza está desplegando su actividad de prevención e inteligencia

somos muy conscientes de que euskadi no está libre de la amenaza

prevenir cualquier tipo de acto violento y evitar que los movimientos yihadistas radicales se puedan reproducir en euskadi y en este punto quiero recordar también que desarrollamos esa labor

nos une el objetivo de avanzar en la integración social y la educación para la convivencia la comunidad islámica se ha manifestado públicamente contra los atentados que se cometen apelando a su religión y está colaborando para prevenir sentimientos que lleven a la radicalización y a las acciones violentas

ni queremos que se pueda llegar a confundir religión con terrorismo en la interpelación que usted ha presentado hace referencia a las medidas para evitar el germen del fanatismo le he citado la necesidad de fortalecer nuestros principios ético y morales ser ejemplares en nuestros posicionamientos públicos

contribuir a destacar nuestra unidad de criterio para erradicar el terrorismo es imprescindible la colaboración institucional y política la prevención la inteligencia y la disposición de los medios y protocolos policiales necesarios y este es nuestro día a día señora llanos además nuestra labor continuada debe ser apostar por una sociedad cohesionada integrada y educada que impida el germen de todo movimiento radical violento y esa es nuestra voluntad

no seré yo quien sobrepase los límites de la prudencia en materia de seguridad creo que las instituciones debemos propiciar la colaboración y así lo está demandado nuestro gobierno mire la semana pasada por primera vez

ha sido un encuentro coyuntural que espero y demando pase a tener carácter estructural las personas representantes de nuestra policía acudieron a la reunión de trabajo

lo hemos reclamado en nuestra condición reconocida y asumida de policía integral el gobierno español debe seguir dando pasos en esta línea conocen la importancia de la presencia de la ertzaintza en los foros de seguridad del espacio schengen y la relevancia del acceso de la ertzaintza a las fuentes de información

son medidas necesarias para garantizar la seguridad y nos gustaría contar con un nuevo espíritu de colaboración por parte del gobierno español del partido popular

finalizo reiterando además de haber observado los puntos cuatro cinco seis y siete del pacto antiyihadista al que usted ha hecho mención

el ámbito de competencias del gobierno vasco por el cual me interpela no así el resto de puntos

sino en lo qué es la aportación a lo que es las medidas para evitar el germen del fanatismo terrorista que pueda implementar el gobierno vasco y reitero los compromisos como gobierno vasco en el ámbito de nuestra competencia compromiso institucional de oposición frontal al terrorismo y de solidaridad activa con las víctimas compromiso policial y de inteligencia todos nuestros recursos de información y prevención

con todas las policías compromiso de solidaridad y cooperación al desarrollo especialmente en aquellos países más azotados

compromiso social para seguir promoviendo políticas de convivencia interreligiosa e intercultural políticas de cohesión integración y participación

promueva el respeto y la convivencia que nos permita avanzar en una autentica cultura de paz en euskadi y en el mundo creo en la prevención y en la seguridad

el respeto a todas las personas y la integración multicultural y asumimos y atendemos todas estas competencias

con rotundidad que la guerra no es el medio para evitar gérmenes fanáticos que den lugar a células yihadistas he declarado mi oposición a la guerra

global y es necesaria una política europea de defensa común que cuente con el respaldo de naciones unidas la experiencia demuestra

con visiones de corto plazo tomadas en ocasiones al calor de decisiones electoralistas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna llanos andrea zurea da hitza

sobre la participación en el pacto antiyihadista porque en el mismo se pone de manifiesto

empezando por los gobiernos y por los parlamentos este pacto es verdad que empezó con dos partidos políticos

vinieron a decir lo mismo que lo importante era la unidad y la acción conjunta

sin embargo compartían lo sustancial usted cree que no puede compartir lo sustancial con ese pacto antiyihadista usted cree

que es el apoyo de su gobierno no puede compartir lo sustancial de ese pacto antiyihadista usted cree que como máxima autoridad en este país usted no puede liderar precisamente la incorporación a ese pacto antiyihadista

porque hablaba en la primera intervención de la importancia de la unidad y del ejemplo que supuso

el gobierno vasco entonces hacía de motor hacía de empuje precisamente para que todos juntos lucháramos contra el terrorismo entonces el acuerdo fue una necesidad porque los ciudadanos

y esa unidad además de importante como le he dicho en mi primera intervención fue fundamental y esa misma unidad que entonces nos exigían los vascos

porque también euskadi está bajo la amenaza yihadista no se trata de solidaridad también euskadi está dentro de la amenaza yihadista desde esa misma experiencia

haber hecho frente al terrorismo de eta el gobierno que usted preside

y de subir a la sociedad vasca a ese movimiento de unidad política que reclama la ciudadanía haber sufrido a eta y haber sido capaces de derrotarla

respecto al terrorismo tenga un significado especial cualitativamente diferente y sería irresponsable créame irresponsable y los ciudadanos no lo entenderían anteponer criterios partidistas conveniencias políticas

y no está de verdad donde tenemos que estar si alguien sabe el valor que tiene

tenga las siglas que tenga ese terrorismo y venga de donde venga somos los vascos aprendido a fuerza de padecer el fanatismo durante muchos años y lo sabe usted

y lo sabe su partido político y lo sabe el partido que apoya a su gobierno de la importancia de aunar fuerzas de acordar medidas de que haya una foto que es algo mucho más que una foto no trivialicemos de que haya una foto de todos los partidos unidos

por qué les cuesta tanto sumarse a ese pacto me gustaría

de aparcar las diferencias que tenga de no dejarse arrastrar por otros objetivos distintos a la obligación de plantarnos todos juntos

que fuera usted capaz como le he dicho antes de ponernos a la vanguardia en la unidad con todos los demócratas que fuera usted capaz de ponernos a los vascos en el lugar que nos corresponde que no es otro que a la cabeza de la unidad política y democrática para luchar contra el terrorismo

y simbólica en este momento es el pacto antiyihadista hágalo señor lehendakari eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señora llanos los ocho puntos del pacto antiyihadista primero cambio del código penal segundo prisión permanente revisable tercero

cuarto mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo quinto garantizar los recursos humanos materiales y económicos necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo sexto poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación

séptimo promover en la unión europea y en las instituciones internacionales políticas de prevención persecución cooperación y sanción penal contra el terrorismo

en las cortes con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria yo me he referido en mi primera intervención a los puntos cuatro cinco seis y siete que creo que son los que corresponden al ámbito de competencias del gobierno vasco

le he trasmitido el compromiso institucional con estos principios que es compartido por el conjunto de la sociedad vasca le he trasmitido el trabajo de prevención y seguridad que está realizando la ertzaintza

mariano rajoy me trasmitió personalmente la información disponible y su objetivo de trabajo compartido en esta materia y por mi parte

y así se lo comuniqué a los máximos representantes o responsables de las formaciones políticas con representación parlamentaria

y lo pueden testificar todos los máximos representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria de cuál es mi disposición incluso para

a mantener la comunicación en función de los acontecimientos y de las iniciativas de carácter institucional que se fueran a plantear hasta hoy

mire ha sido él mismo quien ha reclamado lealtad en la lucha contra el terrorismo yihadista radical y quien ha pedido que no se haga un uso partidista de esta materia y esta es la actitud del lehendakari

lealtad y no uso partidista pretenden ustedes arrogarse la legitimidad única en esta materia y piden explicaciones al gobierno vasco cuando conocen perfectamente nuestra posición institucional que se la he reiterado en la primera intervención partiendo de lo que es las muestras de solidaridad

y lo conocen nuestro compromiso y el trabajo y además que ustedes es que es la sociedad vasca la que conoce la actitud de nuestro gobierno ante el terrorismo y la de cada uno de los partidos políticos y también la del partido popular en euskadi por lo tanto también yo le reclamo señora llanos al partido popular lealtad

espero que la preocupación del partido popular para que el gobierno vasco tome cuantas medidas eviten

incluya apoyar y fortalecer la capacidad propia de actuación incluya la información y colaboración accediendo a las fuentes sobre terrorismo internacional incluya dotar de carácter estructural a un primer encuentro entre políticas integrales que ha tardado más de treinta años en producirse incluya

para la relación coordinada entre los dos gobiernos espero por fin que contribuyan a que el partido popular distinga con claridad la actuación institucional de la iniciativa política señora llanos punto ocho del pacto antiyihadista aplíqueselo

reitero nuestro compromiso integral con todas las medidas a adoptar para evitar gérmenes de fanatismo que den lugar a células yihadistas y contribuir a evitar actos terroristas y no tenga ninguna duda señora llanos de que cuando sea necesaria la apelación a la unidad de las formaciones políticas

lo haré sin ningún tipo de tapujos porque creo en ella y así lo he hecho insisto

y así lo he hecho en las dos ocasiones en las que creo que el gobierno vasco ha liderado

atendiendo de manera absolutamente leal a las formaciones políticas con representación parlamentaria y a las máximas instituciones o a los máximos representantes institucionales

lehendakari el diez de abril de dos mil catorce

aprobó un acuerdo cuyo punto cuarto le instaba a su gobierno a hacer pública la lista de entidades financieras con impago en las comunidades de propietarios

la razón de ser de esta pregunta tiene que ver con el hecho de que los sucesivos informes de cumplimiento de acuerdos parlamentarios no he encontrado explicación alguna a

puede entender la incomodidad para el gobierno de ejecutar este tipo de acuerdos

van a llevar adelante la publicación de listas de morosos cosa que por otra parte me parece muy bien entendemos

se constituyen en mora con las comunidades de vecinos por esa razón es por la que le preguntamos

tras la aprobación de la referida proposición no de ley desde el departamento de empleo y políticas sociales y de manera previa a adoptar cualquier decisión

realizar un informe exhaustivo sobre la situación de la morosidad en las comunidades de propietarios para a través de las fuentes propias conocer el alcance real de esta problemática

un informe del observatorio vasco de la vivienda sobre la morosidad bancaria en las comunidades de propietarios para la realización del estudio estadístico se utilizó como fuente

álava y gipuzkoa a través de las cuales se obtuvieron datos reales de un total de ciento cinco administradores de fincas que en conjunto

de la comunidad autónoma este informe concluyó en primer lugar que doscientos cuarenta y siete de las

es decir el seis coma seis por ciento son entidades financieras propietarias de alguna vivienda de la comunidad en segundo lugar

esto es el seis coma tres por ciento del conjunto de la deuda acumulada que ascendía a tres coma sesenta y ocho millónes de euros

financieras como propietarias de viviendas en el conjunto de las comunidades
de propietarios tal y como se observa a la luz de los datos eskerrik asko

me parece bien de hecho ese acuerdo al que ha hecho referencia también se basa en un informe del observatorio vasco de vivienda

una inmediata corrección se constata la negativa a pagar por parte de las entidades financieras como un comportamiento ampliamente generalizado

este informe del observatorio vasco de vivienda que se tuvo en cuenta

acuerdo en el que se decía finalmente plantéese y

morosas con las comunidades de vecinos usted no me ha respondido a esta cuestión que es nuclear si el gobierno los sucesivos informes estudios y análisis si va a publicar o no porque sería una paradoja también que se pudieran publicar las listas de morosos personas físicas cosa que como digo me parece bien como deberes tributarios

lo llevaría a otro tipo de conductas pero que las personas jurídicas que actúan de esta manera como el propio informe del observatorio vasco de vivienda dice que no se terminen de publicar que no sufran ese escarnio cuando además sería una medida disuasoria para que efectivamente hicieran frente a los pagos porque probablemente el aparecer en esas listas

de disuasión para que dejarán en ese comportamiento y en esa conducta pero usted señor consejero no nos responde a la cuestión planteada de forma muy sucinta y muy esquemática de ahí la pregunta van a publicar es decir

pues en fin serán seguramente más ajustadas a las que en ese otro primer informe el observatorio vasco de vivienda hacía también una estimación las cantidades que daban eran mucho mayores desde luego y el porcentaje de incidencia de esta morosidad frente

pues también hablaba de un porcentaje mayor seguramente esos datos son mas

pero sean los que sean lo que es claramente antisocial es la conducta de esas entidades financieras porque además terminaba diciendo el informe del observatorio vasco de vivienda que está en juego

en un debate que traía este grupo a esta cámara es decir eso también está en juego por lo tanto

se publique esa lista y se dé cumplimiento a ese acuerdo parlamentario por lo tanto le ruego que me responda de forma taxativa si se va a publicar o no

antes de adoptar decisiones como la propuesta por este parlamento y la que usted solicita entendemos que es necesario conocer el alcance real

puesto que a tenor de los datos ofrecidos por la estadística que acabo de mencionar se puede concluir que el peso de la morosidad bancaria en euskadi es menor que la observada a nivel estatal

en el estado y este segundo informe será el que sobre la morosidad bancaria será el que

necesidad de adoptar o no medidas como la propuesta en todo caso el departamento de empleo y políticas sociales al margen de las relaciones privadas que se dan en las comunidades de propietarios y desde la esfera de las políticas públicas de vivienda continuamos y continuaremos impulsando todas las herramientas que posibiliten que las entidades bancarias movilicen que es lo fundamental las viviendas vacías que tengan en stock como los convenios para la puesta de alquiler

que ya se han hecho nos parece que esta labor es mucho más importante a tenor de los datos que tengamos actuaremos en consecuencia

sí gracias presidenta señor lehendakari covite presentó el pasado día diecinueve de octubre una denuncia ante la audiencia nacional setenta y seis presos y expresos de eta por haber supuestamente utilizado documentación falsa con el objetivo de acceder a estudios universitarios en la upv

así sus condenas covite sostiene que los presos presentaron documentos falsos para poder inscribirse y que gracias a ello algunos de los presos consiguieron reducir sus condenas en opinión de covite los presos y los ex presos denunciados han cometido un delito de uso continuado de documentación falsa

del código penal la audiencia nacional recientemente el día diecisiete de noviembre ha admitido a trámite y decidido por tanto investigar la denuncia presentada por covite el juez ha solicitado a la upv de bergara la aportación de los certificados que los presos presentaron

universitaria a través del curso de acceso para mayores de veinticinco años por tanto hay caso y hay materia que investigar lo cierto es que upyd

parlamento una iniciativa parlamentaria para crear una comisión de investigación que pudiera investigar políticamente los hechos denunciados en su momento por covite

y el grupo socialista denunciaron tumbar con sus votos ni siquiera por lo tanto quisieron investigar este gravísimo asunto la pregunta que le hago lehendakari es si el gobierno vasco va a realizar algún tipo de investigación política si va a hacer algo en relación a esta cuestión

o utiliza la afirmación más allá de las acciones judiciales cuando se trata de aclarar judicialmente esta cuestión mire tal y como ha hecho siempre la universidad del país vasco aportará toda la documentación que le sea requerida respetará la resolución y obrará en consecuencia usted mismo ha hecho

formuló de la creación de una comisión de investigación política y el parlamento tal y como también lo ha reflejado usted mismo ha analizado su propuesta y la ha rechazado por la representación que usted ha citado y que supone una amplia mayoría el ochenta y cinco por ciento para ser exactos

el gobierno vasco comparte y asume esta decisión ahora bien usted me está pidiendo lisa y llanamente que incumpla la decisión de este parlamento y yo no lo voy a hacer además usted ha recibido contestación a esta misma cuestión este año y en esta cámara por parte del rector de la universidad de la consejera y de mí mismo

la constitución avala expresamente que el fin de la pena es la reeducación y resocialización

que los estudios realizados por estas personas están garantizados por un protocolo aprobado por unanimidad en el consejo de gobierno

y que este protocolo está ratificado por sentencia doscientos seis barra dos mil once del tribunal constitucional mire ante el procedimiento abierto la universidad y el propio gobierno van a colaborar con todos los requerimientos de la investigación judicial
no pretenda situarse usted por encima de las decisiones judiciales e institucionales señor maneiro eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí señor lehendakari ha habido una novedad en relación a aquel debate desarrollado en esta cámara hace algunos meses y es que en este caso y ante esta nueva denuncia de covite la audiencia nacional efectivamente ha admitido a trámite y decido por tanto investigar

existe esa novedad que el juez va a investigar este caso y nosotros pensamos que se trata de investigar este caso judicialmente pero también

pendiente se trata de investigar efectivamente políticamente también el trato de favor dispensado por determinados elementos de la upv a los presos de eta mientras algunos profesores miraban para otro lado y otros

y tenían que exiliarse por esto me parece un asunto muy relevante y por esto le preguntaba efectivamente qué es lo que va a hacer el gobierno y también si va a apoyar a covite en sus reivindicaciones en todo caso señor lehendakari

un asunto pendiente un asunto muy importante se trata de reconocer y realizar el pertinente homenaje

universitarios que durante años se enfrentaron a eta siendo muchos de ellos exiliados como consecuencia de ello este homenaje oficial todavía no se ha hecho y nosotros en ese sentido vamos a presentar una iniciativa hoy mismo para pedir al gobierno y a la upv que efectivamente realice ese homenaje oficial a esos profesores que lucharon tanto

y además de esto le voy a hacer entrega también hoy de un informe elaborado por maite pagazaurtundua con prólogo de carlos martínez gorriarán y epílogo de fernando savater los profesores de la upv

interesante únicamente he subrayado una frase de este informe una frase de fernando savater aún estamos esperando que se les rinda oficialmente el reconocimiento debido
no por lo que padecieron sino por lo que lucharon como ve usted ese homenaje lo haría eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

vuelve otra vez con que del tiempo que

admitir a trámite y a abordar una investigación judicial usted plantea que además de la investigación judicial tiene que haber una investigación política

hace referencia a los homenajes a los profesores entrar en la senda de homenajes sectoriales me parece que es muy delicado señor maneiro muy delicado todas las víctimas de persecución no solamente las víctimas mortales las víctimas heridas por terrorismo todas las víctimas de persecución

contempladas en lo que han sido también pronunciamientos de este parlamento de los gobiernos vascos anteriores y de lo que han sido actos también en reconocimiento a lo que ha sido el sufrimiento que por persecución han sufrido valga la redundancia muchas personas no solamente los profesores de universidad y hemos tenido

en legislaturas pasadas por lo tanto creo que está manifiestamente expresada la solidaridad del conjunto de las formaciones políticas si no en su totalidad sí en su mayoría

con reiteración y en cada ocasión vuelve a cuestionar también

la honorabilidad sí señor maneiro sea de la universidad pública sea de las instituciones sea de las personas responsables de la gestión

su compromiso con la transparencia y la claridad con que ha ofrecido las explicaciones que se le han demandado también en este foro parlamentario el rigor

y que cuenta con un protocolo aprobado y a él se atiene eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí gracias presidenta señora consejera traigo lo que creo que es un tema novedoso no esencial seguramente pero que sí que consideramos que tiene

unas semanas preguntamos al gobierno sobre la misa dominical emitida por e te be uno cuál era la respuesta del gobierno e i te be informó de que la retransmisión de la misa de ritual católico por el canal e te be uno se viene realizando desde mil novecientos ochenta y seis

y de que es responsabilidad de las autoridades diocesanas la organización y rotación de las mismas

la visibilidad y la riqueza del patrimonio artístico cultural de los templos del país vasco se informa también en esa respuesta escrita de que es una productora externa la que realiza las retransmisiones y de que el costo ha sido de casi tres mil euros por misa en dos mil catorce

en el presente año yo le pregunto señora consejera considera razonable que la televisión pública vasca mantenga en su programación la retrasmisión
dominical teniendo sobre todo en cuenta que vivimos en un estado aconfesional gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

respondiendo a su pregunta señor maneiro creo sinceramente que la emisión de la misa de los domingos por la mañana es mayoritariamente aceptada por la sociedad por quienes las siguen en e te be uno y por quienes no sintonizan con ese programa hay emisiones que están ligadas a un canal y este lo es por veintinueve años de emisión continuada

pero hay situaciones en las que la religión o la tradición ligada a la religión sea uno creyente o no afecta directa o indirectamente a nuestro día a día

autónomo pero en todo caso yo le preguntaba por su opinión y la opinión del gobierno en relación a esta cuestión y efectivamente usted me ha respondido que sí que le parece razonable que e te be uno emita

a nosotros no nos parece razonable que una televisión pública emita misa todos los domingos o fiestas de guardar no nos parece en absoluto razonable

en un estado aconfesional desgraciadamente no vivimos todavía en un estado laico

aconfesional y por lo tanto yo creo que los poderes públicos y también las televisiones públicas las radios públicas deben mantenerse

religiosas y por lo tanto considero que la respuesta dada por este gobierno

pues no tiene el peso suficiente no tiene la justificación suficiente cuando se explica que lo que se pretende

dar a conocer a la ciudadanía vasca el patrimonio artístico de euskadi no tiene ningún sentido que en el año dos mil quince una televisión pública en este caso autonómica emita misa los domingos no tiene ningún sentido ya digo que no vivimos en un estado laico desgraciadamente todavía pero vivimos en un estado aconfesional

debate que creo que nunca se ha tratado en esta cámara pero creo que ya digo es un asunto que tiene su importancia y upyd ha querido traerlo

parlamento veremos qué pasa en el futuro pero en todo caso nuestra posición es esa como partido laico creo que no tiene ningún sentido que una televisión pública emita misa todos los domingos no tiene

o independientemente del coste no tiene ningún sentido y por lo tanto esto es un principio que defendemos en euskadi
y en cualquier parte de españa gracias eskerrik asko maneiro jauna

considero señor maneiro que etb debe tener en cuenta la fidelización de su audiencia y la trayectoria de una emisión hay que tener en cuenta las dieciochocero veintecero personas que cada domingo conectan con la emisión de la misa

o los arrantzales que siempre han solicitado la posibilidad de conectarse desde los barcos para seguir dos programas principalmente la misa y las traineras contenidos que les hace sentirse más cerca de casa

una decisión pero considero que hay que tenerlos en cuenta y la televisión es de todos

eta haien artean eztabaidatzen dituzte edukiak el consejo de administración conoce las líneas maestras de la programación de etb

usted sabe que la parrilla de los diferentes canales de etb se debate y discute en el seno del consejo de administración en ese consejo de administración hay representantes parlamentarios es cierto

este tema en el mismo pero en cualquier caso parece que este asunto no sea prioritario para sus integrantes según parece la emisión de la misa de e te be uno no ha sido cuestionada en el seno del consejo de administración desde la creación del ente pero por no equivocarme lo que sí puede asegurar es que en los últimos años nadie ha cuestionado su emisión ziurtatzen dizut azken urteetan ez duela inork ere ez

siguiendo la misma tal vez tendríamos que eliminar del calendario todas las festividades religiosas eskerrik asko

en definitiva ayudas públicas a empresas sí pero con condiciones claras dejando claro que recibir dinero de la ciudadanía obliga a las empresas a no

dejando claro que incumplir ese compromiso significa tener que devolver todas las ayudas recibidas ese es un nuevo modelo de relación

tengan de aquí en adelante y queremos saber si la consejera comparte esta idea queremos que nos responda a lo que hoy en esta interpelación le hemos planteado en relación

ere hori eta behin behineko neurriak hartzeko asmoa aurkezten zuen decía que la empresa aduce para ello

que se basa en varios aspectos entre ellos habla de la falta de carga de trabajo

afirma que es difícil conseguir mayores cargas de trabajo y en definitiva la empresa se encuentra en una situación complicada desde hace no un año sino varios años el comité de empresa por otra parte con el cual esta semana no nos hemos reunido pero sí en ocasiones anteriores defiende la competitividad de la planta y asegura que hay una voluntad

afirma que hay una estrategia dedicada a hacer desaparecer la carga de trabajo de la planta sin embargo a nuestro juicio en este caso hay un elemento diferenciador

en este país con diferentes situaciones con diferentes situaciones de falta de competitividad de escasa capacidad de producción definitiva de problemas estructurales cuáles son los elementos diferenciadores a nuestro juicio en este caso

uno que no se ha presentado ni se ha planteado un elemento de planificación a largo plazo que ataje los problemas estructurales

y abogue por mejorar la situación de competitividad no solo basada en costes laborales sino en otros muchos aspectos y luego me detendré en ellos si tengo tiempo sino que además de todo eso anuncia al mismo tiempo la creación de una serie de puestos de trabajo en otro lugar un número similar de puestos de trabajo en ese sentido entendemos como gobierno que eso no es una práctica desde luego

sabiendo que quizá para la empresa desde su punto de vista privado era más fácil actuar así y generar puestos de trabajo

y que difícilmente eso podría ser llevado a cabo en vitoria en berantevilla en un plazo corto de tiempo eso lo entendemos pero sin embargo

llevado a cabo el anuncio de la coincidencia del ere con la creación de puestos de trabajo entendíamos que desde luego

y provocaba que esa negociación que se tenía que dar no se podía llevar a cabo en las mejores condiciones un proceso negociador por el que el gobierno aboga por el que además

para hacer que se pudiera llegar a un buen término

sin embargo creemos que en estos momentos que se ha retirado ese ere es el momento en el que hay que empezar a trabajar hay que empezar a analizar esa planificación a largo plazo para darle competitividad a esa empresa

que esa empresa se ubique en berantevilla y continúe trabajando con la actividad que tiene ahora y quizá con alguna nueva actividad que se modernice que entre en procesos automáticos que de alguna forma se gane en competitividad y que se pueda conseguir carga de trabajo no existe el aspecto del ere desde luego el planteamiento del ere de extinción fue una situación que provocó que se generara un problema que tenía que haberse abordado de una forma diferente entendemos que ahora nos da tiempo a todos pero sobre todo

acuerdos que sean suficientes acordados y que desde luego garanticen la continuidad de la planta y no conduzcan

situaciones de alguna forma drásticas en cuanto a medidas que se tengan que tomar en esa empresa es el momento del diálogo de verdad del diálogo y de que el comité de empresa

el gobierno estará en la medida que tenga que estar para ayudar y colaborar en que eso sea una realidad me hablaba usted de las ayudas públicas y ya de verdad es que estamos mezclándolo la mayor parte de las empresas de este país podemos decir que alrededor de un noventa por ciento recibe ayudas diferentes diferentes y lo dije en la anterior ocasión pero no me cansaré de repetirlo

en este caso el grupo en su conjunto ha recibido diez coma cinco millónes de euros en los últimos años no más

cómo se financian y cómo son esas ayudas públicas esas ayudas públicas no nos habilitan para intervenir en el ámbito privado de la empresa es más

buscan incentivar la competitividad de una empresa buscan conseguir que sea mucho más productiva buscan mejorar esa empresa pero no siempre lo consiguen

no son suficientes son necesarias pero no suficientes y las ayudas públicas no son un conchaveo por supuesto no son te doy la ayuda para que hagas esto

tienen objetivos específicos y están reguladas específicamente para conseguir esos objetivos de acuerdo con la normativa europea como el resto de países

que haya que actuar de una determinada forma como usted dice eso no europa nos dice cómo lo tenemos que hacer y por supuesto en este país lo hemos hecho durante mucho tiempo

reconocidamente muy bien por todos los ámbitos internacionales otra cosa son

ayudas no voy a decir prestamos que se dan a empresas para realizar inversiones que son prestamos

sí van unidas a la generación de empleo y a la generación de inversión esas sí pero no estamos hablando de esas

concretamente en la planta de berantevilla le voy a decir más ha recibido en los últimos años únicamente

significa que aproximadamente en siete años han recibido cuarenta mil euros por año y eso sí nos da de alguna forma una pista

en la consecución de sus nuevas tareas de poder abordar nuevos proyectos de nuevos proyectos de ingeniería de nuevas actividades

no ha sido quizá toda la que debería de haber sido es ahí donde hemos hablado con la empresa y donde hemos planteado la posibilidad de que se trabaje ese plan a largo plazo que sea presentado al comité de empresa

ser abordado en profundidad ese es el único compromiso que hemos adoptado con la empresa y la empresa vino a explicar cuál había sido su proceder durante este tiempo

sus posturas y su posicionamiento respecto a lo que se había hecho y a partir de ahora nos toca trabajar a todos pero sobre todo insisto en el ámbito privado

imprescindible para darle continuidad a la planta de berantevilla eskerrik asko

gaztelaniaz y por tanto el gobierno va a seguir haciendo lo que tiene que hacer no se va a poner en el lugar ni del comité de empresa ni del empresario en ninguno de los dos ahora bien

al señor gandásegui más estructural que necesita abordar otro tipo de aspectos para que de verdad el compromiso que él presenta

aquí en euskadi se pueda llevar acabo requiere una planificación que queremos compartir y que queremos seguir en eso sí y vamos a estar viéndola y siguiéndola de primera mano y

multilocalizada como tantas otras en euskadi que gracias en muchas ocasiones

ha permitido continuar a las empresas abiertas que hay cosas que mejorar por supuesto

dicho y seguiremos diciendo compartida por todos trabajadores equipo directivo y empresario o empresaria guste o no guste ese es el modelo de modernidad al que tenemos que avanzar y el gobierno tiene que ayudar a
que eso sea una realidad y ahí nos van a encontrar siempre eskerrik asko eskerrik asko

hoy se celebra el viernes negro y la mayoría de los comerciantes también en nuestro país

porque realmente para ellos la mayoría de los días son negros porque el comercio en general está pasando días semanas meses un periodo tal y como ha publicado ha hecho público una de las principales asociaciones de comercio de esta comunidad autónoma en el periodo de llamada crisis entre dos mil ochenta y ocho y dos mil catorce

y cinco mil establecimientos comerciales la mayoría de ellos

en este país y muchos la gran mayoría de los que sobreviven sobre todo en el espacio de los pequeños viven una autentica economía de guerra

mientras vemos que las compañías del ibex han ganado este año ya en lo que va de año

vemos que no es que la tarta crezca para todos sino que todo lo que crece la tarta se lo llevan los grandes y parte de lo que antes se llevaban los pequeños se lo llevan también los grandes

en el reparto de las rentas desciende permanentemente y desciendo porque hay políticas públicas económicas

la reforma laboral la reducción de salarios las políticas fiscales regresivas beraz

desegokiek beraz arlo horretan en el ámbito de la política macroeconómica

una política basada en la fiscalidad progresiva y en la promoción del empleo estable y de los salarios justos bakarrik ondo eta behar bezala banatzen baldin bada aberastasuna

los reales decretos del gobierno central de madrid siempre del gobierno de madrid siempre con la intención de ampliar horarios de liberalizar horarios con una u otra excusa la más importante las cuales es la de la generación de zonas de gran afluencia turística vemos como el gobierno vasco ha recogido el guante ampliar todavía el ámbito de aplicación de estos decretos desarrollando una modificación específica de la ley de comercio que permita extender aún más de lo que los reales decretos de madrid proponían la existencia de zonas de gran afluencia turística vemos como el tribunal supremo de madrid ha dejado sin efecto

que tenía esta comunidad sobre la proliferación indiscriminada

para evitar esta proliferación indiscriminada

semanas al hilo del debate presupuestario hemos podido encontrarnos con una discriminación fragrante e inaceptable hacia el sector del comercio

se dedica una cantidad ínfima para un sector que representa prácticamente o está en torno al diez por ciento del producto interior bruto y del empleo y para el cual se dedican unos escasos trece

en una economía y en una sociedad dinámica se van generando como los cambios en los hábitos del consumo la aparición del comercio electrónico la multiplicación de franquicias problemas que es natural

con la debida importancia con la debida contundencia con la debida dedicación de recursos en proporción a lo que como decía antes supone este sector

por tanto y en resumen tenemos un cuadro un cuadro de problemáticas que están aquejando al pequeño comercio y ante las cuales pensamos que no se está actuando

energía en el ámbito macroeconómico evidentemente la crisis en general el paro la política fiscal regresiva la falta de empleo la precariedad del empleo y el descenso de salarios

como el comercio electrónico y las franquicias tenemos políticas públicas que en vez de apoyar están siendo negativas como los reales decretos de madrid de liberalización de horarios los cambios de la ley de actividad comercial

o la marginación presupuestaria que padece el sector ante este cuadro que es casi un cuadro clínico un cuadro de problemáticas que se refleja en un descenso del empleo en este sector
qué es lo que está haciendo o pretende hacer su gobierno eskerrik asko casanova jauna

pero en este momento el concepto de competitividad desde luego se extiende a todos esos entornos donde se está desarrollando el comercio

cada vez a más compradores tratando de satisfacer las necesidades que se están buscando y ante esta situación

en entornos urbanos que permitieran mantener en cada uno de esos entornos la actividad estamos apoyando a través de financiación pero no solo de financiación

en todo este sector comercial pero además apoyando algo que consideramos importante que es el relevo generacional y la transmisión empresarial es decir tratando de facilitar que todos esos pequeños comercios que tenían riesgo de desaparecer

porque no existe relevo generacional porque no se quiere continuar en una situación tan compleja fueran a cerrar y a desaparecer y ahí sí quiero destacar y agradecer públicamente al sector

para detectar dónde existen esas posibilidades y buscar las personas que se pueden hacer cargo de esas empresas pero aun así voy a detallar una serie de aspectos que con esos

en marcha al programa de ayudas hirigune donde se destacan estrategias zonales de cooperación y dinamización tratando de poner en marcha en diferentes municipios y hemos conseguido llegar a cincuenta y tres donde existía

tratamos de que prevalezca y que continúe funcionando ayudas a la modernización de establecimientos comerciales que ha atendido

con una inversión inducida de más de veintiséis millónes de euros también hemos dotado

que les permita trabajar en asesoramiento tecnológico de esos comercios que trabajen además

cuatrocientos comercios que están de alguna forma tutelados no me gusta la expresión pero ayudados para que incorporen las tecnologías de información y comunicaciones para que trabajen nuevos modelos de negocio y que se ha conseguido llegar a más de setecientos comerciantes vascos en esta edición última pero además quisiera

que no se limita a dar ayudas sino que posibilita el que existan más de doscientos empresarias y empresarios que se han interesado por poner en marcha ese relevo generacional y que hoy podemos decir que a lo largo del año ya hemos conseguido doce casos de éxito en transmisión empresarial y que han evitado ese cierre de esos comercios pero insisto trabajando ya con doscientos iniciativas además hemos puesto

de los tres territorios en el que hemos buscado el nuevo mapa de necesidades formativas en comercio que nos ha permitido junto con lanbide poder abordar directamente esas necesidades formativas y poderlas ofrecer de acuerdo con el mapa que se ha realizado que entendemos que es realmente interesante

que nos permite conocer realmente cuál es la situación de los establecimientos comerciales de hostelería y de turismo en euskadi es decir no es suficiente tener

qué está ocurriendo en ese comercio está abierto realmente cómo se encuentra y ello nos va a permitir además poder poner otras medidas de apoyo sectores no solo de comercio sino de hostelería y turismo dedicados a la parte más pequeña a las más pymes de esas zonas comerciales o de esos comercios

establecimientos turísticos o establecimientos de hostelería en definitiva

los propios sectores pero donde no coincido con usted bajo ningún concepto

la liberalización de horarios comerciales que impone madrid lo he dicho en esta cámara el gobierno vasco ha recurrido esta ley pero lo que además queremos hacer es garantizar

indiscriminada a todo el territorio por tanto lo que estamos buscando es salvaguardar el principio de no liberalización y sobre todo y lo más importante hacerlo de acuerdo con los municipios y con el sector es decir no se produce ninguna autorización análisis ligado a esa afluencia turística de la que usted hablaba si no hay acuerdo con el sector y si no hay acuerdo del pleno municipal luego

la modificación que estamos emprendiendo y desde luego si algo creemos es que tenemos que ayudar al sector porque usted me hablaba de medidas macro de fiscalidad

si no garantizamos que estos comercios permanezcan les ayudamos a que exista un relevo generacional no habrá empleo ni de calidad ni de no calidad no existirá ese empleo y lo que creo que todos tratamos de hacer es de que ese empleo exista y se mantenga

afronte las nuevas situaciones a las que nos estamos enfrentando cada día más

nuevas formas de comprar y antes de terminar esta primera ronda sí me gustaría hacer hincapié en un aspecto que lo he dicho de pasada al inicio

de todos y cada uno de los que nos dedicamos a ir a estos comercios porque también la responsabilidad en cómo actuamos en cada uno de ellos cuáles son nuestros hábitos de compra hace que ellos actúen de una forma o de otra tenemos que ayudarles pero también ser responsables
con nuestras actitudes y nuestras formas de comprar eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea casanova jauna zurea da hitza

a responderle por quizás la cuestión más polémica que es la de los horarios aunque quizás no le guste la alusión pero aquí su partido está utilizando lo que podíamos ya llamar técnica del fracking y no es la perforación de pozos en las aceras de los comercios

pero desde el ayuntamiento de bilbao se presiona y se hace trabajo de lobby en madrid para que bilbao también sea influida en los reales decretos que obligan a en determinadas ciudades

o dicen que están en contra de la liberalización de horarios perdón de la y en donosti acaban de decretar la extensión de la

corporación anterior con precisamente consenso del sector

incide en el sector de comercio está en el ámbito de sus competencias ni en las competencias de esta cámara son problemáticas complejas algunas de grado macroeconómico

que superan digamos nuestras competencias nuestras posibilidades de intervención pero sí hay un margen amplio de intervención y es sobre ese margen de intervención donde no se está actuando

y con la debida dedicación de recursos porque yo creo que las cosas hay que decirlas claras trece millónes usted me ha podido desgranar

un buen rato pero hay una absoluta desproporción entre trece millónes y el diez por ciento del empleo que están más o menos

una desproporción que es inadmisible nuestro grupo ha presentado una enmienda dentro de los presupuestos que eran difíciles de corregir porque

pero para aumentar el cincuenta por ciento como mínimo y como una señal de que hay un compromiso para este sector de cincuenta por ciento de la partida dedicada al comercio interior porque entre otras cosas hablaba

y a esos proyectos hasta a esos proyectos se les está racaneando que son proyectos

instrumentos útiles para conocer y mejorar y hasta esos están teniendo que pelear por cada euro cuando realmente son apuestas estratégicas que no deberían tener ningún problema presupuestario nosotros venimos a pedir precisamente eso que se dote de recursos que se dé protagonismo al asociacionismo para el diagnóstico para generar una estrategia

codiseñada entre todos los agentes y también las instituciones y entre los agentes incluyo a los sindicatos a ellos a ver si se les va a preguntar también la cuestión de la liberalización de horarios porque ellos representan a los trabajadores y trabajadoras que van a tener que trabajar

pero ese diseño tiene que ser conjunto y ese diseño tiene que estar dotado de recursos tiene que haber un diagnóstico compartido

que no entre en la guerra de grandes contra pequeños de centro contra periferia de ciudad capital contra

que aúne y que intente dar solución y respuesta a las necesidades que son diferentes por eso

están en barbecho de las mesas sectoriales de las mesas

al conjunto del sector pedimos también que nos aclare qué va a pasar con el pts de equipamientos comerciales

de deferencia de tres meses esperando que su gobierno se dignara a trasladar a la sociedad o al sector alguna reflexión sobre lo que piensa hacer ante esta nueva situación generada

hemos solicitado ayer mismo la comparecencia de usted misma o de la consejera de medio ambiente y ordenación territorial para que nos explique a nosotros y a la sociedad qué es lo que piensa hacer

proponemos que se doten como decía antes de mecanismo de debate y también de recursos económicos para la formación para la transmisión para hacer frente a las nuevas realidades del mundo del comercio para generar sinergias también en el pequeño comercio

realidades que tienen más recursos económicos financieros para poder trabajar desde el pequeño comercio también

de descuento etcétera etcétera pensamos que los bonos y planes de apoyo a la compra los planes renove llámese de una manera u otra en diferentes sectores son planes que funcionan y han funcionado también en este pero claro ahí también se necesitan recursos

la puesta en valor la sensibilización hace falta campañas hace falta que la gente

este pequeño comercio buscamos también la especialización la diferenciación la defensa del patrimonio comercial histórico la implicación del pequeño comercio también en el comercio electrónico puede ser parte de él y no ser un rival efectivamente necesitamos

señor casanova por empezar por el principio me dice que nuestro grupo en madrid ha intentado que bilbao entre es que bilbao estaba desde el principio bilbao ha estado siempre

léase usted las cosas porque si no es que estamos equivocando los conceptos bilbao ha estado desde el principio como zona de gran afluencia turística

que como siempre y en esta modificación de la ley de actividad comercial hemos tratado de introducir el acuerdo con los municipios y en este caso usted dice bilbao ha mantenido lo que existía en el caso anterior y donosti antes gobernada por la coalición a la que usted representa mientras me hace esta interpelación

luego a ustedes también les pareció bien porque si no nos hubieran dicho que no la abriéramos

y ahora pretende veladamente veladamente porque aquella se hizo con consenso pues esta también ahora el gobierno municipal ha decidido hacer otra cosa con consenso también porque sino de otra forma no lo hubiera hecho pero usted siempre veladamente introduce aspectos como lo del fracking que no viene a cuento de verdad de verdad que

viene aquí pero es que no viene a cuento para nada en la actividad comercial es que no hay forma de que hagamos una interpelación en serio y hablemos de lo que hay que hablar

hablemos de qué es más importante el asociacionismo o

le he interpretado mal pero desde luego lo que nosotros pretendemos hacer es

existe un plan estratégico de comercio existe luego no me lo pida porque ya está donde todas esas medidas que usted cita que si campañas que si acciones que si diferenciación están todas

el plan que desde el departamento se ha preparado la ley de actividad comercial es que de verdad sabemos de qué estamos hablando sabemos qué estamos trabajando

si no hay acuerdo en el municipio no pasa nada pasamos por ahí y usted sabe perfectamente que el pequeño comercio en muchísimos municipios de euskadi en muchísimos

que quiere por tanto vamos a intentar regular y garantizar que esas personas que quieren hacerlo lo hagan bajo la mejor de las maneras hay un tema

y la situación a la que nos ha abocado ahora el recurso y la aceptación y la última sentencia evidentemente ahí hay que analizarlo muy despacio lo hemos debatido en alguna ocasión lo hemos comentado en alguna ocasión no en esa cámara y tanto el departamento de

pero usted comprenderá que dado que no podemos echar para atrás esa sentencia en estos momentos lo que se puede hacer es bastante limitado y en eso estamos trabajando no tenga ninguna duda

le contaremos hasta donde hemos llegado pero vamos a ser un poquito serios si me lo permite y vamos a trabajar con ese comercio que de verdad necesita que le ayudemos

en la mesa de comercio que existe esa mesa de comercio también representada en la mesa de turismo por cierto donde se habla

con todos los agentes y la parte sindical como usted me comentaba va a ser consultada en la ley de actividad comercial pues hasta donde yo sé las leyes se tramitan bajo una determinada vamos a decir una determinada regulación y se atiende a todos

si yo no lo he entendido mal después de analizar quienes han presentado luego vamos a poner todas las cosas sobre la mesa y analizarlas todas tanto lo que se refiere a la ley de actividad comercial que no venía a cuento en esta interpelación pero se lo digo

porque ese plan estratégico que se haya elaborado dentro de la mesa de comercio sea todo lo mejorable que se